de nuevo moción sobre hiriko mi intención no es hablar de lo que ya se debatió en su momento no es hablar tampoco de la comisión de investigación no es mirar demasiado al menos hacia atrás expresar qué es lo que en nuestra opinión debería hacer el gobierno vasco a partir de los datos que ya conocemos de ahí la moción que nosotros en su momento nosotros lo que proponíamos era que este parlamento instara al gobierno a personarse como acusación particular en la causa judicial abierta en el juzgado de instrucción número tres de vitoria contra varios de los promotores del fracasado proyecto automovilístico hiriko instar también al gobierno a emprender cuantas acciones sean necesarias para recuperar

donde se podrían haber cometido delitos de malversación falsedad documental fraude a la administración fraude de subvenciones públicas apropiación indebida y blanqueo de

una de las recomendaciones que ya realizó la comisión de investigación sobre epsilon e hiriko ya se aprobó por tanto aunque parece obvio que conviene recordarlo y volver a plantearlo en el día de hoy a esta moción se han planteado cuatro enmiendas y si dejamos al margen la del partido nacionalista vasco

semejantes por eso hemos sido capaces de llegar a una transaccional aunque únicamente firmada por el partido socialista y por el partido

por el resto de grupos de la oposición en todo caso veremos qué es lo que dice cada uno de ellos finalmente hemos firmado una transaccional ya digo con el grupo socialista para instar al gobierno a personarse como perjudicado en la querella formulada por la fiscalía provincial de álava ante el juzgado de instrucción número tres de vitoria contra varios de los promotores del fracasado proyecto

proponemos instar al gobierno a cumplir las recomendaciones incluidas

y a emprender cuantas medidas sean necesarias para recuperar los fondos públicos concedidos por dicho gobierno respecto a los que una sentencia determine que se ha hecho un uso no permitido

proponemos instar al gobierno a que se reúna con los trabajadores del proyecto hiriko que no han recibido el dinero que les deben las empresas promotoras y que defienda los derechos de los trabajadores en el desarrollo de la causa abierta en los juzgados creo sinceramente que vista la transaccional que hemos alcanzado todos los grupos de la cámara podrían firmar o al menos votar a favor de esta transaccional incluso el propio grupo nacionalistas

ya digo que ahí está la comisión de investigación de epsilon e hiriko impulsada en su momento por upyd ahí están las conclusiones y las recomendaciones que se realizaron

malgastados en lo que se refiere a epsilon y a hiriko en relación a hiriko el contundente informe de la fiscalía de álava desvela que los

de euros catorce coma siete millónes del gobierno de españa y dos coma siete del gobierno vasco y que idearon un plan se dice literalmente para lucrarse

con el pretexto de un proyecto de un vehículo eléctrico que iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos señala que se creó una red de sociedades para recibir las ayudas con veintidós contratos o facturas presuntamente ficticias

de euros como ejemplos uno de los empresarios utilizó la subvención obtenida para alquilar

de la tasación y se auto contrató la reforma del local por trescientos diez mil novecientos sesenta euros o la compra de un prototipo

a que este vehículo no tenía aplicación alguna para hiriko

formalizado con la empresa denokinn para trabajos que no fueron realizados y que tuvieron

euros técnicos del gobierno vasco han reconocido ante el parlamento que es

logre más del cincuenta por ciento de financiación pública

hiriko de gravísimos delitos hiriko recibió dos coma siete millónes de euros del gobierno vasco durante los años dos mil diez dos mil once y dos mil doce hiriko recibió además cerca de quince millónes de euros del gobierno de españa consecuencia de una serie de negociaciones

nacionalista vasco la titular del juzgado número tres de vitoria admite a trámite la querella planteada por la fiscalía de álava contra seis empresarios y la asociación

un plan para apropiarse de fondos públicos en su propio beneficio

estamos hablando otra vez de malversación de caudales públicos de falsedad documental de fraude a la administración de fraude de subvenciones públicas de apropiación

el fiscal califica a hiriko como una trama societaria que dilapidó dinero público otra vez en este caso los acusados son personas vinculadas

una red para sustraer fondos públicos y sostiene que seis empresarios erigieron un entramado societario que les permitía hacerse con hipotéticos beneficios y eludir cualquier posible pérdida el fiscal acusa a los promotores de hiriko de crearlo solo

y les acusa como decía antes de delitos gravísimos de ahí nuestra interpelación de ahí nuestra moción y finalmente de ahí la transaccional que firmado con el grupo socialista por qué es por lo que planteamos instar al gobierno a personarse como perjudicado en la querella formulada por la fiscalía

y por decencia política y porque el gobierno de españa ya ha anunciado que se personará como acusación particular lo cierto es que el gobierno vasco viene repitiendo que no ve

y justificado para personarse aunque dice pueda hacerlo a posteriori en el curso de la instrucción nosotros no estamos de acuerdo pensamos que lo razonable

ya y participar en todo el proceso de instrucción como una parte más y dar esa imagen de que efectivamente si quiere conocer la verdad y de que el gobierno y el conjunto de la ciudadanía ha sido perjudicada por todas esas actuaciones pensamos que es lo más razonable y lo que exige la decencia que quede claro y deje claro el gobierno que le importa este asunto y que se siente perjudicada creo que hay datos sobrados para pedírselo y por qué pedimos lo que pedimos en el segundo punto pues porque ya se pidió a través del dictamen de la comisión correspondiente

para recuperar los fondos públicos concedidos por dicho gobierno añadiendo en este caso respecto a los que una sentencia determine que se ha hecho un uso no permitido de los mismos entiendo que en este punto y puesto que está redactada la transaccional de esa forma el grupo nacionalistas vascos no debería de tener

a favor al menos de ese punto además incluimos en la transaccional la exigencia al gobierno de que cumpla las recomendaciones incluidas en el dictamen de la comisión de investigación e incluimos también la referencia a los trabajadores víctimas destacadas de lo que nosotros consideramos una estafa y a las que obviamente no podíamos olvidar esa es por lo tanto la transaccional que hemos firmado con el grupo socialista llamo a todos los grupos sin excepción a votar a favor

de una querella del fiscal por lo tanto yo tampoco voy a reproducir toda la historia

la posición del partido socialista que es la posición de este parlamento y situarnos en el escenario que ha avanzado con esa querella

en este asunto de hiriko hay dos partes bien diferenciadas y distintas una corresponde a las características de las subvenciones de las administraciones públicas

de esos fondos empezando por esta en este parlamento ya hemos concluido que los promotores de ese proyecto hicieron un mal uso de los fondos públicos por varios motivos algunos muy llamativos como que unos señores sin experiencia previa en automoción

un joyero un publicista y un exconcejal vieran una oportunidad de negocio que se les había pasado por alto a empresas

pero eso sí sin poner un euro de su bolsillo todo con dinero público con dinero de los ciudadanos todo esto indica la poca seriedad empresarial de la propuesta porque era un proyecto basado exclusivamente en el uso de subvenciones

de esos fondos en beneficio propio no para el fin al que estaban destinados tenemos un proyecto mas relacionado con la picaresca que con la seriedad acreditada de los empresarios vascos y este asunto el delictivo

en la querella que ha formulado contra varios de los promotores del proyecto hiriko

de distraer fondos públicos en su propio beneficio y esta es la cuestión a resaltar en el estado de la cuestión hoy es decir unas personas privadas

que trataron según el fiscal de distraer fondos públicos en su propio beneficio buscando más el apoyo de las distintas administraciones que el éxito por el acierto empresarial no hay más que leer la querella para entender todo esto en la querella el fiscal se refiere a malversación de caudales públicos

fraude de subvenciones públicas apropiación indebida y blanqueo de capitales en fin por eso el gobierno vasco no puede mirar para otro lado pero en cualquier caso

y comprobar todo eso como por ejemplo los flujos de dinero en las operaciones entre las sociedades que constituían ese consorcio

para conocer los hechos probados respecto a la actuación de los promotores de hiriko y entonces según lo que diga la sentencia

nosotros se lo exigiríamos si así fuera en cuanto a la otra parte la de la administración las subvenciones de hiriko se han tramitado como el resto como las que van a cualquier empresa

a las que se presentan muchas empresas todos los años se han hecho también en régimen competitivo

a un proyecto empresarial además el total de esas subvenciones del gobierno vasco no ha sido elevado dos coma sesenta y cinco millónes de euros

y se han dado a distintas empresas del consorcio hiriko para proyectos concretos de desarrollo tecnológico y en cuanto a cómo se desarrolló todo el trámite de esas subvenciones tiene interés el dictamen recoge que el principio de prudencia y de rigor en la inversión del dinero público llevó al gobierno vasco a utilizar el criterio de aprobación

porque las empresas del consorcio cambiaban con frecuencia y este hecho no daba una seguridad suficiente por eso en la convocatoria etorgai de dos mil diez

y en la convocatoria de dos mil once otra vez por anualidad no por tres años como correspondía a la convocatoria se dieron novecientos seis mil euros finalmente en dos mil doce

se solicitaba y por año en total dos coma sesenta y cinco millónes de euros además de otras ayudas de menor cuantía en definitiva

por el contrario lo que sí ha habido es una mala actuación de personas que desde la actividad privada

el proyecto hiriko el caso es que el control de las subvenciones del gobierno vasco ha sido exhaustivo repito y que el tribunal vasco de cuentas públicas debe emitir informe ya antes del verano lo que zanjará definitivamente la fiscalización de estos fondos

del gobierno de españa lo analiza el tribunal de cuentas del reino por eso nos parece buena la transacción que hemos

como que la personación del gobierno vasco se haga como perjudicado no presuponemos ningún resultado

muy razonable también el que el gobierno vasco haga todo lo necesario y recordarlo para cumplir las conclusiones de y recuperar los fondos si fuera el caso de que a las subvenciones del gobierno vasco les afectara la sentencia y por fin incluir una perspectiva introducida por otro grupo

creo que está recordado todo y que hay una garantía en este procedimiento también para no creer ahora mismo

cuando haya una sentencia judicial y es que la mejor garantía

de los intereses públicos está en que es el fiscal el defensor de lo público quien ha interpuesto la querella penal
por este asunto nada más gracias eskerrik asko reyes jauna

muchas gracias señora presidenta con brevedad puesto que

trasladados aquí por el señor maneiro y el señor reyes en relación con la cuestión que nos atañe en este momento como comparto los argumentos de los trabajadores de hiriko que el otro día denunciaban la desaparición de material que costó tres millónes de euros

con mucha preocupación y atención las actuaciones realizadas por el fiscal y la juez en relación con este asunto querella y admisión a trámite por la juez de instrucción número tres del juzgado de vitoria

como entiendo muy útil la decisión del tribunal de cuentas del estado de realizar la fiscalización de afypaida y denokinn en relación con las subvenciones concedidas en torno al proyecto hiriko y como también comparto y compartimos el interés del gobierno de españa

ayudas que se concedieron lógicamente a la vista de estas cuestiones y a la vista de lo tratado y analizado por este mismo parlamento también compartimos

lo que no entiendo yo es la actitud del gobierno vasco otro asunto que parece que se lo quieren quitar de encima

el gobierno vasco del partido nacionalista vasco dio dinero público para esta iniciativa para hiriko y el partido nacionalista vasco negoció dinero público del ministerio para la financiación de este fallido proyecto

en total entre unas administraciones y otras además no solo debemos centrarnos en un delito

o apropiación indebida no hay otros entre ellos

fraude a la administración y eso le apela directamente a la administración

concurrentes en la financiación de este proyecto fallido fraude a la administración es uno de los delitos o sea que en ese sentido la administración vasca se tiene que sentir llamada a participar en ese proceso o en ese trámite judicial que se

como de sentido común de cajón por eso y por interés también por ejemplaridad como hablábamos antes en el primer punto el gobierno vasco debe de estar presente en estas actuaciones que ya vemos que le afectan y que hay que tomar todas las medidas para que actuaciones como estas no se vuelvan a producir yo creo que el gobierno vasco lo debe hacer lo hará

va a ser apoyada y aprobada y yo creo que tendrá que hacerlo forzosamente y en ese sentido la enmienda de transacción en clara y es sencilla el parlamento vasco

está claro eso ya han hablado también mis compañeros anteriores cumplir las recomendaciones bueno eso está bien y además hay que hacerlo ya lo hemos visto en otros procesos y algo que nos parece importante puesto que tiene una dimensión especial y además los propios trabajadores están aportando consideraciones muy importantes en relación

en relación con algunas de sus preocupaciones que han manifestado públicamente y que lo quieren hacer también al gobierno o que lo deben hacer al gobierno y en ese sentido

diga que aquí alguien pretende traer el caso hiriko de nuevo a esta cámara por intereses puramente electoralistas voy a intentar desmontar esa argumentación de manera preventiva

de posible corrupción política en el que se ven mezclados intereses públicos con intereses puramente privados de los promotores del proyecto hiriko

enpresari batzuei batzuen alde no es un proyecto fracasado más bien lo contrario hiriko cumplió los objetivos

a una serie de empresarios amigos y personas afiliadas al pnv

los empresarios promotores de este proyecto no pusieron apenas dinero de sus bolsillos confiaban y sabían que ese proyecto sería financiado

el pnv negoció en madrid con el gobierno del psoe las partidas más importantes que fueron destinadas al proyecto las personas que están detrás del proyecto participaron

sobre las actuaciones que realizaron los promotores carecían de ningún tipo de experiencia en el sector aún así tuvieron un relación preferente en su trato con las administraciones públicas

la razón estaban avalados políticamente por el pnv todos los promotores son personas del partido

reconocidas por su afiliación política al pnv hori da errealitatea eta horregatik

electoralistas hay que recordarle que fueron sus motivos electoralistas los que propiciaron que pactaran con el pse que la comisión de investigación fuese limitada y no pudiesemos acceder a todas las comparecencias que algunos grupo pedimos

han sido realizados casi medio año después de las conclusiones de la comisión de investigación y que por sus intereses electoralistas hemos padecido el oscurantismo y eh bildu se tuvo que personar para que las patentes no se perdiesen en manos de otros empresarios que aspiran a rentabilizar el dinero público invertido gaur gaurkoz oraindik ere galdera asko jarraitzen dute

jakinmina asetzen hace unas cuantas semanas la consejera tapia decía que el proyecto hiriko había cumplido los objetivos ante tal declaración interesada

sobre lo que iba a ser el proyecto no se utilizaban por parte de ninguna empresa del automóvil aun teniéndolas desarrolladas debido a que no podían ser homologadas en ningún país por las diferentes legislaciones

no servía para absolutamente nada cuando nos hablaba del plegado del coche le dijimos que ese desarrollo ya había sido desarrollado por el mit por lo que de innovación nada de nada pero qué objetivos se pudo cumplir si el coche ni tan siquiera andaba hala ere sailburuak jarraitu

hace un mes un parlamentario del pnv en una entrevista defendía la figura de los promotores aceptando que son conocidos suyos y que tienen un pasado ejemplar

a que mire quién es jesús echave en cuántas empresas participa los sectores industriales de dichas empresas cuántas contrataciones públicas tienen etcétera

no sería suficiente se autoalquiló un local propiedad de otra de sus múltiples empresas por un precio

lo renovó con dinero público se vendió a sí mismo vino a través de su bodega para los eventos que organizaba también se autofacturaba vamos que solo con eso nos podemos hacer a la idea de si es un ejemplo de empresario o un empresario favorecido por sus contratos políticos

karrantzako minden kasua no son casos aislados todo está conectado y es que por lo que parece el pnv ha confundido

internas de su partido con las instituciones públicas considerando las instituciones públicas como una ramificación más de los propios intereses de su partido hoy presentamos una enmienda a la totalidad a la propuesta inicial presentada por el grupo misto

mejor lo sucedido y lo que se pretende con esta propuesta nuestro punto tres y cuatro vienen a añadir más contenido a la original

e intangibles los activos tangibles son todos aquellos elementos materiales que fueron comprados mediante las subvenciones públicas así aparecen en los balances coches furgonetas

etcétera estos tangibles nos gustaría saber por dónde están

que no estén siendo utilizados por otras empresas en la actualidad con fines ajenos por lo que fueron concedidas las subvenciones tal y como ya han denunciado

los activos intangibles son aquellos que los ingenieros definieron en la comisión de investigación como aquellos conocimientos y desarrollos que permitirían el desarrollo de un modelo similar al hiriko

mucho nos tememos que de no vigilar eso estos conocimientos estén siendo utilizados de manera gratuita por las empresas

en desarrollar a través de esos activos intangibles un proyecto similar fuera de euskal herria el punto cuatro pretende cumplir una promesa como la que se les hizo a los y las trabajadoras de hiriko por parte de este gobierno

reunirse con ellos también pedimos que el gobierno tal y como ha hecho en otros casos defienda los intereses de los y las trabajadoras y defienda el derecho de los mismos a que se les paguen

que se les adeuda por supuesto no hablamos de aquellos trabajadores de hiriko

de cerrar el proyecto hiriko encontraron acomodo

de aquellos que sí tenían ilusión en que el proyecto pudiese ser viable hablamos de ellos y de ellas no de los otros en relación a la enmienda transaccionada

el punto de los y las trabajadoras que en definitiva era el punto cuatro de nuestra enmienda a la totalidad pero pediríamos si puede ser

el tercero de los puntos que es el vigilar los activos que fueron subvencionados y pagados con dinero público ya que seguramente será la única forma de recuperar el dinero que se les adeuda a los y las trabajadoras esa es la única forma de recuperar el dinero

o el poco dinero que puedan tener afypaida en sus cuentas es la única forma de que pague y también sobre todo si pedimos que

los activos de afypaida y que vele por la recuperación de su dinero tendremos que defender a aquellos activos que han podido ser desviados de la propia asociación o entidad sin ánimo de lucro afypaida y velar por ellos y su recuperación a modo de resumen

y por ir acabando diré que hiriko nació para ser un proyecto fracasado porque el objetivo único que perseguía

repartirse el dinero y salir corriendo tal y como hicieron eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eguerdi on guztioi no es la primera vez que traigo a colación pero señor maneiro es usted un maestro en la aplicación de la teoría del caos aquella que debate cómo un posible aleteo de una mariposa en kansas

termina en tsunami en melbourne porque si en euskadi

un asunto como el de hoy hiriko que había que haber debatido el día veintiséis lo hemos trasladado dos o tres semanas después por qué esta teoría del caos tiene una explicación se ve

le resultaban imprescindibles para sacar adelante este tema

para intentar convertirlos en sus servicios auxiliares de cuando realmente es usted el que se ha convertido en su

y todo porque su único objetivo es seguir hablando del asunto y sacudir al pnv verdadera obsesión suya y de casi todo

cuando usted lo que debería estar es mirando a los ciudadanos en general y en particular a ciudadanos

sobre las que usted y otros están echando lodo permanentemente recrean en todos los casos que van tratando si no se resuelve punible resulta que todos callarán y no pedirán disculpas

es absolutamente injusto ni siquiera voy a profundizar mucho

de aquella comisión de investigación que nos encargamos permanentemente en torpedear en la que yo me he sentido

como alguien que colaboró con una causa del latrocinio a manos llenas y por tanto como cooperador necesario para ello

no voy a enfadarme sobre todo porque estoy haciendo un esfuerzo

de tensión nerviosa ahora que estoy dejando de fumar por recomendación de osakidetza y también por un interés intentar lograr un nuevo escaño para estar entre todos nosotros la próxima legislatura pues voy a intentar no enfadarme por esa acusación de cooperador

una comisión dure un par de años para recorrer en su trabajo varias campañas electorales y cientos de portadas

no puede ser y no le permito que me pueda dar una lección de democracia cuando usted se negó a votar

se negó a votar que documentos que teníamos en las manos y que nos había remitido la empresa y el órgano correspondiente no habían llegado ni los teníamos le niego cualquier posibilidad de intentar debilitar ni a mí ni al grupo parlamentario nacionalista ni al pnv aduciendo que pretendimos bloquear una comisión

a quien se negó a aprobar que el tribunal vasco de cuentas por dos veces aprobó una gestión administrativa y nos envió los papeles firmados para demostrarlo la democracia maneiro es aprender a comer con la misma cara de satisfacción un queso de idiazabal y un sapo pero

porque insisto hay que comérselo todo siempre que responda a la verdad

a otros para obviar objetivas verdades democratizar un relato perverso

ahora ya habida cuenta de que el fiscal en plena campaña preelectoral a puesto en manos de la justicia el asunto y digo con todo el catálogo de acusaciones vuelven de nuevo a la carga no valen las explicaciones que les puedan dar y que respondan a verdades objetivas no no valen porque no responden al guión que usted y otros han escrito previamente

que es usted el que lo mantiene en marcha usted ayudado por sus equipos auxiliares

a lo que nos estamos refiriendo aquí aurrekontu guztiak gauzatu ondoren administrazioak betetzeak egiaztatu zituen

si las inspecciones de ejecución fueron correctas como en las decenas de proyectos de las mismas convocatorias y de momento nadie dice que no fue así no hay motivo para personarse

y si el proceso penal está además en su proceso embrionario en el que ni siquiera se han hecho diligencias de investigación

no se justifica una personación del gobierno vasco de hecho para que sepan y yo no soy de la profesión jurídica pero me he ilustrado lo que he podido la personación en una causa penal solo puede hacerse con una acusación concreta y no para estar allí de cotilleo como sí se puede hacer en un contencioso

de los fondos concedidos por el gobierno vasco y por tanto de mala gestión de quien controló esas ayudas pues vayan allá pero sepan que no han ido en nuestra voluntad acusar de gestión culpable al anterior gobierno vasco para nada que es quien otorgó y fiscalizó aquellas ayudas y que según los datos que obran en manos del actual departamento en principio se hicieron de una manera correcta

que el juzgado haga y que habrá cambios de los que ahora tenemos y eso lo saben ustedes se puedan detectar gestiones incorrectas o delitos de diferentes índole entonces será el momento de personarse si no

responder más que a un impulso político de enredar donde no corresponde porque están ustedes seguros de que se van a mantener todas las acusaciones inicialmente

baldintza horietan diru laguntza itzultzea eskatzea algo han avanzado por la senda de la objetividad transaccionar un texto en el que se solicita la devolución del dinero

sentencia determine que no se ha hecho un uso correcto del mismo se les ha deslizado la idea de que puede que las cosas no se hicieran mal ahora eso sí

ese punto están incurriendo en una contradicción porque solicitan en el mismo párrafo cumplir la recomendación del dictamen de la ponencia que textualmente dice el parlamento insta al gobierno a que formalice la petición de devolución de las ayudas y subvenciones concebidas a afypaida por un lado a ver si se me están ablandando

y ahora solo según sentencia todo en el mismo párrafo porque si piden acudir como perjudicado contra empresas es que presuponen un mal uso luego a qué pedir devolución solo en función de una sentencia si ya han sentenciado que lo han ejecutado mal

su interés no es pedir que el gobierno vasco vele por el dinero público que lo hace y ustedes lo saben su interés

veracidad absoluta a una acusación de un fiscal y acrecentar tal veracidad empujando al gobierno a acusar la verdad es que usted la presunción de inocencia perdónenme la arrugan la trocean la lidian y se hacen un puro con ella

a la que todos deben adherirse y sino se les acusa de sucia connivencia solo les pido

cojan a algunos fiscales analicen las acusaciones que han podido hacer y crúcenlas luego con las sentencias definitivas

que ustedes en su obsesión política de buscar enemigos

que proyectos de investigación fallidos en el mundo mundial dijo isabel allende aquello de que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla
tengo la sensación de que ustedes no son de los que quieren correr riesgos muchas gracias eskerrik asko tellería jauna erantzunen

sí gracias presidenta lo que está bastante claro es que si alguien no quiere buscar la verdad

es el partido nacionalista vasco que se niega persistentemente a poner en marcha todas las comisiones de investigación en los últimos tiempos y que incluso cuando se ponen en marcha

a los hechos puedo remitirme porque fue exactamente así y el partido nacionalista vasco trató de boicotear esta comisión de investigación de la que por cierto yo

al pasado sino que lo que he dicho es lo que en nuestra opinión y en opinión de la mayoría de este parlamento el gobierno vasco gracias a los grupos que van a votar a favor de esta transaccional gracias especialmente al grupo socialista que es el que ha firmado esta transaccional pero también al resto de grupos que entiendo yo finalmente van a votar a favor de ella no sé si de este modo abrazan la teoría del caos

pero desde luego es evidente que hemos logrado a través de las negociaciones pertinentes y a través de nuestra insistencia política lograr más apoyos que el partido nacionalista vasco

como en otras ocasiones hemos logrado el apoyo del resto de grupos pero debe ser que todos estamos equivocados menos el partido nacionalista vasco mi obsesión

así lo pueda parecer lo cierto es que lo que yo personalmente hago y upyd hace en este parlamento es controlar al gobierno vasco

la acción del gobierno de españa esa es nuestra obligación no es nuestro propósito sacudir al partido nacionalista vasco aunque desde luego motivos hay

del gobierno y observar qué es exactamente lo que se ha hecho mal no pospusimos la moción como consecuencia de que los representantes de eh bildu

un grupo de esta cámara en concreto un parlamentario del partido popular

porque faltaban dos parlamentarios del partido popular que estaban ausentes por enfermedad con el resto de los votos y con el voto supuestamente del representante

hubiéramos ganado la votación esa es la realidad si hubieran estado

la moción por ello porque faltaban dos representantes del partido popular por enfermedad tampoco tengo yo gran interés en ganar siempre todas las votaciones

lo que me interesa es defender una serie de principios y una serie de ideas y efectivamente nosotros creemos en esta transaccional que finalmente hemos firmado me parece que es de hecho

alguna cuestión más que podría ser de interés pero me parece que lo reflejado aquí es algo de sentido común de mínimos efectivamente pedimos al gobierno que se persone

efectivamente el gobierno vasco no quiere personarse como perjudicado para no dar la sensación de que quizás los controles no se efectuaron correctamente esto es lo que dijo la consejera en su momento para no dar esa sensación sin embargo ustedes mismos reconocen que quizás después podrían personarse en función cómo vayan los acontecimientos es decir son ustedes los que se han deslizado o han deslizado la idea de que igual no se realizaron correctamente los controles

por pedagogía política y democrática lo correcto es que el gobierno se persone como perjudicado en esa querella desde luego pedimos que se cumplan todas las recomendaciones del dictamen de aquella comisión y que se recuperen los fondos públicos concedidos por dicho gobierno respecto a los que una sentencia determine que se ha hecho un uso no permitido de los mismos y que defienda

en el desarrollo de la causa abierta en los juzgados qué hay de malo en todo esto señores del partido nacionalista vasco una transaccional perfectamente razonable

que el fiscal califica a hiriko como una trama societaria que dilapidó dinero público no es el propio fiscal el que dice esto o es acaso upyd en su soledad la que defiende

una red para sustraer fondos públicos cuáles son los delitos por los que se les imputa son delitos que han sido inventados por upyd estamos hablando de malversación de caudales públicos de falsedad documental de fraude a la administración

de blanqueo de capitales acusaciones lo suficientemente importantes como para que el gobierno vasco efectivamente se moje no mire para otro lado y diga que este asunto es de su incumbencia y de su interés

han sido perjudicados los ciudadanos vascos como consecuencia del uso indebido realizado por estos promotores de esos fondos públicos

creo que efectivamente estamos hablando de un posible caso de corrupción política pero en todo caso la justicia será

sentencia en todo caso creo que esto es lo que debe hacer a día de hoy el gobierno vasco

la acción del gobierno creo que esta transaccional saldrá adelante y por lo tanto

gracias señora presidenta la verdad señor tellería que no pensaba intervenir

por aclarar algunos de los argumentos que usted ha utilizado respecto a los firmantes o aquellos que apoyen

primero quiero afirmar antes de nada el empeño del partido socialista de aclarar y velar

en este caso concreto en hiriko por ejemplo como estamos

desde el gobierno socialista con su actuación prudente rigurosa de control como este grupo parlamentario en la comisión de investigación

y sin que haya ninguna posibilidad de haber avanzado más en el dictamen porque el propio dictamen dice

el del tribunal de cuentas del reino que falta el conocer entre el entramado societario

de los que nos se podía disponer y por eso ahora en un proceso judicial

podrá avanzarse en el análisis de esos asuntos y cuando conozcamos los informes de los tribunales de cuentas en lo que concluyan pero aún así con los datos que tenemos

contundentes y a la vez respetuosos con la presunción de inocencia este grupo

en la defensa de los bienes públicos ni respetuosos con la presunción de inocencia pero lo que no se puede decir señor tellería es que

a la querella del fiscal porque lo contrario es mucho peor lo que no se puede hacer entendemos es que el fiscal

de delitos muy graves a una serie de personas en relación al uso de fondos públicos y el gobierno vasco o este parlamento que analiza este asunto mire para otro lado si el fiscal dice es razonable que el gobierno vasco como afectado no acusando a nadie y puede se persone en la causa

ha hecho bien y eso está comprobado el seguimiento riguroso de las subvenciones

que no afecte a la subvención del gobierno vasco lo que encuentre si encuentra algo el fiscal en cuanto a malversación de fondos fraude en el uso de fondos públicos puede ocurrir eso

o puede ocurrir que ese entramado societario haya engañado a uno a los dos o a los dos gobiernos en el uso de los fondos pero eso si es así

un proceso judicial es decir en lo que no ha habido error es en el control de los gobiernos vascos respecto a los productos tecnológicos desarrollados y eso está bien luego cuál es el problema el fiscal muy seriamente de uso fraudulento de usos públicos qué problema tiene el que el gobierno vasco como posible afectado se incorpore sin acusar a nadie

ninguno creo que no somos los que firmamos hoy una proposición en defensa del uso de los fondos públicos de la defensa

quien debe dar explicaciones ante lo que tiene el fiscal publicado

quien debe de decir explicar lo que hace gracias eskerrik asko reyes jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

sí muchas gracias presidenta las conclusiones de la comisión de investigación decían que las relaciones económicas entre las asociaciones

han mencionado las empresas consorciadas subcontratadas suponen un complicado enjambre de operaciones

el fiscal y el juez en relación con ese tema es decir dar pasos necesarios que ya habíamos percibido nosotros

política parlamentaria pero que está bien claro que demuestran que hay mucho como también la fiscalización del tribunal de cuentas del estado que es necesario

ahí están las cuestiones de fondo señor tellería

yo tenía una compañera y un compañero que estaban ausentes por enfermedad en ese pleno y le dije que

si seguía el punto se iba a perder y en ese sentido

lógicamente le dije tú verás gorka

una oportunidad de hablarlo porque no sabíamos algunos de los posicionamientos pero si sabíamos

pero con la ausencia justificada de mis compañeros

pasan muy a menudo y es lógico yo creo que con normalidad ustedes podrían haber votado esta iniciativa con absoluta normalidad

las actuaciones administrativas de las que hemos hablado en los trabajadores como objeto de atención pública

y esa sí se justifica se justifica esencialmente además

es decir dos de los delitos fraude a la administración fraude a la administración

la personación porque se está apelando a las administraciones a sus subvenciones a sus dineros públicos y a la actuación administrativa es decir ya decidirá el juez por otro lado si considera necesaria o procedente o no la personación

que eres perjudicado a tí te interesa el caso y el juez dice

fraude a las administraciones públicas fraude en subvenciones públicas muchas gracias

nadie torpedeó la comisión de investigación yo creo que es faltar por lo menos a la verdad me gustaría

sobre hiriko y si alguien tiene a bien decir también si es normal o no es normal que un informe del tribunal vasco de cuentas sobre algo que se está investigando políticamente en la comisión de investigación

aportado posteriormente a las conclusiones o a que la comisión de investigación sacase sus propias conclusiones es normal o no es normal a nuestro parecer no es normal

ni correcto o por lo menos no debería serlo se ha hablado de que el proyecto en sí nadie cuestiona que sea un proyecto que estuviese fracasado yo creo que no se ha entendido

es un proyecto fracasado desde el inicio porque no existía proyecto y le vuelvo a recordar las roboruedas no podían ser homologadas con lo cual se estaba haciendo una inversión en algo que no servía para absolutamente nada los desarrollos del plegado ya existían por parte del se estaba pagando por algo que ya existía

pagar por hacer bicicletas voladoras el problema quizá esta en el modelo

proyectos que no sirven para absolutamente nada y que no queremos ningún tipo de viabilidad para los mismos quizá lo que deberíamos es empezar a pensar en qué modelo tenemos y si todo es subvencionable a nivel industrial todo lo que no va a ser

es subvencionable quizá este debate debamos empezar a tenerlo quizá sea el debate a tener en cuenta porque si lo que podemos llegar a subvencionar desde las arcas públicas es cualquier pedrada de cualquier empresario que luego no va a poder comercializarse qué casualidad siempre que esos empresarios también puedan tener cierta cercanía política a unos partidos políticos u a otros podemos cerrar ya

porque quizá se trate de eso en definitiva quizá lo que se trate es de poder dar dinero

o sin que ellos tengan que validar un proyecto

y este coche ni servía para nada y sobre todo todo aquello que se estaba desarrollando ya existía o no se podía homologar y ahí está el problema realmente el proyecto no servía para absolutamente nada

se tratan o se traen a votación en definitiva no son más que el cumplimiento de la recomendación de la comisión o parte de ellas conocemos

sobre el caso de miguel cuál va a ser la posición del grupo nacionalista

o a lo que aquí se vaya a votar en el parlamento pero sí es una muestra también de volver a constatar que el problema no es un problema ya del gobierno vasco es un problema del partido nacionalista vasco es un problema serio que tiene el partido nacionalista vasco porque vuelvo a decir le crecen los enanos y cada vez que ha perdido el control de unas instituciones o cada vez se investiga algo salen casos a relucir

me alegro bastante por el contrario es que el punto de los trabajadores se haya aceptado y es de agradecer porque son ellos

o darle viabilidad a ese proyecto empresarial son ellos los que trabajaron y desarrollaron por lo menos algunos de los trabajos y son ellos y ellas las que hoy por hoy no han cobrado absolutamente nada le pediría al señor lehendakari

la consejera tapia hace ya dos años les dijo que se iban a reunir ustedes como gobierno en eso por lo menos comprométanse

también les aclararán muchas de las posiciones que por lo menos ellos y ellas tienen bastante claro en relación que fue el proyecto hiriko para que sirvió el proyecto hiriko
y sobre todo en la situación en la que se han quedado muchos de ellos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen

bai eskerrik asko mahi buru andrea mire señor reyes usted ha dicho en la primera intervención

creo que de fiscal pero que vieron una oportunidad de negocio

y yo me pregunto si eso es tan claro y tan obvio y eso está mal además

que no sabían nada de coches ni de electricidad algo de culpabilidad debe de haber ahí y otra cosa señor

hay tangibles hay intangibles hay que vigilar los tangibles o intangibles o estaban haciendo

en gipuzkoa hay qué vigilar algo

es todo un cumulo de contradicciones por cierto los trabajadores de hiriko sí han cobrado algo de hecho pactaron cobrar para no demandar

diga la verdad han cobrado algo que tiene que cobrarlo todo por supuesto yo soy el primero que va a exigir que cobren todo pero usted aquí ha dicho que no han cobrado y cobraron y usted lo sabe para empezar nadie se ha dirigido a mí

con una transacción y no para negociar sino para esto es lo que ahí vale ustedes querían dejar fuera al pnv está bien les voy a insisto en que

creo que solo hay una acusación de la fiscalía que puede modificarse creo que en estos momentos los datos que obran en manos del gobierno vasco es que se hizo correctamente las ayudas y la fiscalización y por tanto no entendemos que haya que presentarse no obstante el segundo punto aun habiendo avisado de la contradicción en la que entra en el texto pero entendiendo que se ha modificado de una manera correcta en la orientación de decir que se cobre cuando se demuestre que se ha gestionado mal

y en el tercer punto cómo no recibir el gobierno vasco y este y el parlamento a los trabajadores de hiriko

ese punto miren voy a repetir algo que mi compañera

pero porque creo que merece la pena decirlo respecto a cómo se está gestionando este asunto la pasada legislatura en aquella larga

sin vivir de temas usted señor maneiro el diez de mayo del dos mil doce

que se creó un burdo sistema de espionaje controlado por un dirigente del pnv

con no se sabe exactamente qué fines fin de la cita sabe

en que usted aseguró la fehaciente demostración de unos hechos que una juez ha dicho que fehacientemente para nada están fehacientemente demostrados

aquí le espero a que si usted atiende siempre a la fehaciente verdad

venga a este foro y diga que no tuvo fehacientemente razón que acusó falsamente que no se adhirió y sigue sin hacerlo al principio de presunción de inocencia y que fehacientemente mintió porque no estaba aquello fehacientemente demostrado aquí le espero yo fehacientemente

siempre apelando a la justicia pues si quiere justicia

y a los fehacientemente otros miren porque acaba de haber una sentencia de un juez

porque dice que es una sentencia de intuición subjetiva

si uno ve incluso sus enmiendas a esta proposición no de ley usted señor maneiro dice el proyecto hiriko dónde se podrían haber no

y porque al parecer en ese proyecto se cometieron porque al parecer

es más les voy a decir la teoría del caos trae esto porque al haberse retrasado

hoy mismo y es que

acudió al senado americano para acusar de comunistas a personas que trabajaban en el departamento de estado diciendo que puedo decir que no tengo mucha información

que desacredite sus conexiones comunistas el macartismo o argumentum

ya desaparecido de usos y costumbres lo acaban de recuperar y resumidamente vendría a ser ningún informe afirma rotundamente que resulta imposible que sean ladrones luego son ladrones amen pues fíjense de hoy mismo dieciséis de febrero

número tres de vitoria que dice se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al delito del fraude a las administraciones y dice en su segundo fundamento de derecho

pero lo he entendido perfectamente lo que resulta insostenible es que los hechos descritos en la querella puedan incardinarse en un delito de fraude a la administración y al artículo cuatro punto tres punto seis y cuatro punto tres punto ocho del código penal ni la más

permite la interpretación que del tipo efectúa el ministerio

niegan la proporcionalidad restan oportunidad y congruencia al operativo policial esas son las razones que supuestamente justifican la actuación policial

con la utilización de los lanzapelotas la velocidad con la que se disparan esos proyectiles la contundencia con la que golpean lo hacen absolutamente

un puñetazo va rápido pero no tanto añadía que desde el punto de vista médico no se puede considerar de baja letalidad incluso puede causar

la desproporción no es una mera hipótesis de laboratorio como atestigua la presencia hoy aquí

de sus víctimas mortales pero es que además la falta de precisión del impacto lo hacen absolutamente indiscriminado y por lo tanto inoportuno

con esos supuestos fines antidisturbios tanto el alcance por disparo directo como por rebote es absolutamente aleatorio efecto de la suerte con la experiencia con la que hoy contamos seguiremos hablando de mala suerte de accidente de error evitable de echo fortuito

es elegida por puro azar ellas mismas han dicho gráficamente que es una ruleta rusa el proyectil de caucho elige a su víctima

debekatu ditzan cuarto argumento los daños que han generado las pelotas de goma no reciben ningún tipo de reconocimiento y de reparación en justicia

público o de que estaban demasiado próximos derivado de que se les imputa a ellos la culpa del daño o tal vez su error estar en un lugar equivocado o tal vez derivado de la fatalidad de que no se puede identificar al perpetrador lo cierto es que no hay ni un solo caso en el que estas lesiones gravísimas incluida la muerte haya encontrado un reproche

no hasta la fecha la justicia ha sido ciega ante estos materiales la historia de los daños producidos por las pelotas de goma en ciudadanas y ciudadanos vascos

evidencia que no hay daño lamentablemente la verdad jurídica la verdad judicial no se corresponde con la verdad real con la verdad de la calle el informe de víctimas de vulneración de derechos humanos de motivación política de dos mil ocho recoge casos que efectivamente no han recibido una respuesta de la administración de justicia ese informe duerme hoy el sueño de los justos pero señala casos que están pendientes casos con los que y la justicia están todavía en deuda cinco su prohibición es necesaria como medida de no repetición no sé en qué circunstancias se permitirán o para qué situaciones se reservarán los lanza pero lo único que sé es que la mera restricción a los hechos que nos estamos refiriendo se podrán repetir también en el futuro

su uso cómo aparezca esta recogida en las instrucciones internas de la ertzaintza

que no conoceremos que no podremos evaluar porque esas instrucciones seguirán siendo reservadas y se nos seguirá negando el acceso

que investiga el único caso hoy abierto por utilización de pelotas de goma el caso iñigo

una excepción que parece más bien deja su evaluación en manos de la propia policía recientemente uno de los pocos disturbios que hemos conocido agentes demandaban volver a emplear este material

quién dirige la ertzaintza los agentes quienes

emplear los mandos intermedios que deciden entrar con todo los sindicatos los medios de comunicación que les dan cobertura y que magnifican esa demanda quién es el responsable

las responsabilidades desde otro punto de vista quién quien tiene esa actitud irresponsable hay que conjurar definitivamente esa posibilidad de que se reproduzca el daño causado por las pelotas de goma definitivamente y para siempre porque lo demandan sus víctimas cuando hablan de su tragedia porque no podemos tolerar que en nuestras calles la policía siga jugando con fuego aunque solo sea en determinadas situaciones en circunstancias restringidas

tal vez se mejora la estadística pero no se evita el riesgo porque tal vez se reducen los boletos pero se mantiene la macabra lotería solo la prohibición la retirada definitiva e incondicional de este armamento puede conllevar la garantía de que no volverán a generar

adoptó la siguiente resolución se ha de iniciar inmediatamente la retirada de las pelotas de goma que se han de sustituir gradualmente de manera que en la fecha de treinta de abril de dos mil catorce es decir cuatro meses más tarde de que se adopta esta resolución sea efectiva

total prohibición total el detonante para que se adoptara esta declaración fue una manifestación que realizó en comisión una oftalmóloga que había tratado heridas de pelota de goma

no estamos acostumbrados a ver pacientes con lesiones de guerra con esta decisión adoptada en cataluña la isla de territorios que mantienen este armamento se reduce aún más nos cerca más por qué no podemos adoptar una decisión semejante cuando además los daños que se han verificado en este pueblo son aún mucho mas

séptimo argumento porque hoy hay una mayoría social y una mayoría política y una mayoría institucional y también hay una mayoría parlamentaria que puede

no la había entonces el pnv demandaba la prohibición concretamente mikel martínez decía el partido nacionalista vasco considera que ha llegado el momento de eliminar totalmente y de manera definitiva

y lo creemos y estamos convencidos porque así lo recomiendan diferentes instituciones internacionales

el ararteko movimientos sociales porque así también nos lo está reclamando la propia sociedad vasca antes estaba en la oposición hoy es el responsable de la ertzaintza entonces no se pudo aprobar aquella

pero hoy hay una mayoría el pnv ha retirado hoy su enmienda escucharé detenidamente por qué lo hace y cual es la

ahora cuando se demuestra que no hay motivo de grave confrontación

que lo justifique y mas bien hay una demanda social que pide que también la policía vasca se adecue a los nuevos tiempos no podemos no movernos no podemos mantenernos en una posición que era mala

y que hoy es peor octavo y último porque estamos en otro tiempo por responsabilidad ante él

una nueva actitud no es compatible con hacerlo con los viejos

porque este parlamento no puede dar legitimidad y dar cobertura política al lanzamiento de pelotas de goma porque sería trágico que un hecho similar a los ya acontecidos pudiera ahora repetirse además al amparo de una decisión del parlamento vasco

adelante porque es el momento de retirar sin condiciones este material que tanto daño y sufrimiento ha causado y que de no tomarse las medidas adecuadas volverá

que se ha determinado mortífero y letal por sus víctimas eskerrik asko arzuaga jauna

buenos días a todos bien señorías los socialistas vamos a votar la enmienda que hemos transaccionado con upyd que lo que dice es que no se usen se retiren se prohíban se restrinjan

las pelotas de goma y que se sustituyan por otros medios no letales menos dañinos para las personas y sobre todo y muy importante se forme y capacite a todos los agentes de la ertzaintza en el correcto manejo y utilización de esos sistemas porque aunque

quiero pensar en la bondad de la iniciativa que hoy nos trae bildu

no se aleja tanto de nuestra posición hay que empezar por afirmar señorías

nunca se ha garantizado el ejercicio de las libertades

y esa y no otra es la labor de una policía integral como la que tenemos y digo que quiero pensar en la bondad de esa iniciativa porque cuando se quiere poner siempre en el punto de mira la labor de las personas que garantizan

me retrotraigo indefectiblemente a tiempos no pretéritos señorías

entraba como de rondón pero era en definitiva el meollo de la cuestión era esa afirmación antigua desfasada y sobre todo miserable de que la policía

nuestra policía integral democrática al servicio de todos nosotros de toda la ciudadanía sigue siendo una policía represiva cómo era aquello de la txakurrada los cipallos etcétera que no tienen nada mejor que hacer

reprimir y coartar la libertad de la población de euskal herria para ser exactos de la población de una parte de euskal herria porque hasta la fecha salvo que yo esté confundida la ertzaintza carece de todo tipo de competencias en francia

como saben no es la primera vez que debatimos este asunto como

allá por junio del dos mil doce como digo debatimos una iniciativa similar y es de justicia reseñar que como consecuencia de los trágicos y lamentables sucesos que provocaron el doloroso fallecimiento de iñigo cabacas el gobierno socialista

y que se ha mantenido hasta ahora pero que como ya manifestamos en su momento y creo que lo dejamos claro meridianamente claro como el agua clara eran provisionales

de las pelotas de goma estaba prevista de manera paulatina así que

y si se hubiese atendido exactamente a lo planteado propuesto y apostado por el gobierno y el grupo socialista este asunto estaría definitivamente resuelto hace meses

estaríamos debatiendo otra cosa y no esto si hoy estamos donde estamos señorías y vamos a llegar a donde vamos a llegar que espero que lleguemos a algún sitio es porque este proceso lo inició como digo para llegar hasta aquí con sentido y con responsabilidad el gobierno socialista

todos recordarán el consejero ares anunció la restricción de manera importante del uso de ese material antidisturbios con fecha uno de enero estaba prevista la prohibición de todas las unidades de seguridad ciudadana

del uso una vez se produjera la transición y se sustituyeran por nuevos elementos de control de disturbios capaces de limitar al máximo el riesgo de cualquier lesión a las personas el once de mayo además de ese mismo año el viceconsejero de seguridad señor

la instrucción interna que regulaba la utilización de este material

han pasado tres años desde entonces y en estos tres años qué ha hecho el actual gobierno señorías aparte de mantener las medidas

puso el gobierno socialista y no seguir con las que así mismo estaban previstas por ese gobierno nada absolutamente nada conviene recordar lo que decía entonces el grupo nacionalista

ha hecho mención el portavoz de eh bildu para el pnv ha llegado el momento de eliminar totalmente y de manera definitiva el uso de pelotas por parte de la ertzaintza siempre se ha dicho señorías que somos

tiramos de proverbios para confirmar realidades entonces el grupo

de doble moral y sobre todo por intereses electoralistas quiero creer

y con la alegría de los inconscientes la ertzaintza saliera a la calle para enfrentarse a graves problemas de orden público con una mano delante y otra detrás

con las manos en los bolsillos como quien se va de potes en dos años y medio casi que han pasado desde la constitución de este gobierno no se ha hecho nada salvo llevar las relaciones del departamento con la ertzaintza a sus mayores cotas

no se ha tomado ninguna medida efectiva ninguna medida clara para la sustitución definitiva del material por mecanismos alternativos que permitan a los agentes

para la seguridad de las personas y bienes públicos y privados

nada ahora hoy parece que efectivamente el grupo nacionalista que soporta al gobierno

ha retirado su enmienda y va a aprobar la transaccional firmada con upyd bienvenidos al trabajo y a la responsabilidad

para ver que efectivamente se ejecuta y se cumple esto que se dice

rigurosa impecable y no se puede decir a esto que no si efectivamente lo que queremos es que inmediatamente se retiren las pelotas de goma y creo que no se puede rechazar

por nadie y la apelación es expresa para el grupo de eh bildu recuerden aquello que les decía de la bondad de la iniciativa les pido
el apoyo de la cámara eskerrik asko gallastegui anderea

presidenta efectivamente las pelotas de goma son el proyectil básico de los cuerpos policiales antidisturbios en españa aunque la comisión europea recomendó su desaparición para finales de dos mil doce son noventa gramos de caucho macizo

de setecientos veinte kilómetros por hora el joven iñigo cabacas falleció en bilbao por los daños causados por el impacto de una pelota de goma en su cabeza disparada por un agente de la ertzaintza el entonces consejero de interior

anunció en su momento y en sede parlamentaria que las escopetas lanzapelotas dejarían de utilizarse el uno de enero de dos mil trece efectivamente han pasado ya más

de su material antidisturbios con lanzaderas más precisas y otros proyectiles

y con el paso del tiempo efectivamente las pelotas de goma dejarían definitivamente

dicen los expertos que recomiendan su retirada que las pelotas de goma son peligrosas su trayectoria es aleatoria y causan daños graves a las personas

y de la guardia civil obliga a disparar contra las extremidades inferiores a una distancia mínima de cincuenta metros y con previo rebote en el suelo además

en los últimos tiempos en cualquier caso su uso debería ser la última opción para disolver

violenta según el mismo protocolo el sindicato unificado de policía no ha solicitado su retirada cree que el uso de pelotas de goma es necesario

excepcionales su portavoz explica que por ejemplo no se utilizaron durante las protestas estudiantiles en valencia ya que deben darse circunstancias de franca hostilidad el asunto también se ha tratado en el congreso de los diputados donde izquierda unida registró una pregunta por escrito en la que pedía al gobierno que aclarara si pensaba renunciar

disturbios o manifestaciones ciudadanas fuente del ministerio del interior explicaron que por el momento

de los efectivos antidisturbios de la policía y la guardia civil aunque se mantiene una actitud abierta de mejora

de los medios existentes entre los defensores de las pelotas de goma están quienes aseguran que son imprescindibles para poder disuadir a suficiente distancia actos violentos sin tener que llegar al cuerpo a cuerpo situación que eleva habitualmente el número de heridos entre los policías y entre los manifestantes

es que en escenarios de intervención como cascos urbanos cerrados su posibilidad de rebote hace más efectiva la disuasión ya digo que son argumentos de los que dicen que

necesarias los cuerpos antidisturbios italianos y griegos

elementos que según los especialistas disminuyen la distancia para repeler el contacto

entre manifestantes y policías los alemanes tampoco lo incluyen en su material aunque el número de agentes por manifestante es mucho mayor que los países periféricos

y francia sí se utilizan las pelotas de goma sin embargo los agentes galos han cambiado su material por unas lanzaderas mucho más precisas

termino con tres apuntes en nuestra opinión es

que eh bildu diga las cosas que dice en la justificación de su iniciativa cuando señala que por ejemplo este material supone un grave riesgo

contra la población de euskal herria no podemos admitir que esto lo diga eh bildu una formación política que sigue sin condenar a eta el mayor riesgo que han tenido y que han padecido los ciudadanos vascos han sido las acciones criminales

que eh bildu defienda lo que defiende en esa iniciativa y que

en esa justificación de esa iniciativa dos la policía debe tener instrumentos para defenderse es el único cuerpo legitimado para el uso de la violencia y como dice la ley de policía vasca debe usar la fuerza de forma legítima de forma proporcional y tres

cuyo riesgo sea cero por tanto habrá que elegir ese material que sea eficaz y que mejor garantice la seguridad de los agentes y de las esto es lo que proponemos en nuestra enmienda que finalmente ha sido la base para afirmar una enmienda de transacción con el grupo socialista efectivamente planteamos en nuestra enmienda la supresión definitiva y en todas las unidades de la ertzaintza

hay que dar a los agentes un material que sea eficaz pero que garantice la seguridad de los propios agentes y obviamente del conjunto de la ciudadanía registramos la iniciativa que registramos en su momento para instar al departamento de seguridad que sustituya definitivamente el uso de las pelotas de goma antidisturbios

realizar correcta y eficazmente su labor y proponemos instar

para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos

como ante el desarrollo de actos violentos creo que esta enmienda ha sido no solamente la base para afirmar una transaccional con el grupo socialista que finalmente va a salir aprobada

el voto de upyd o la presencia de upyd en esta cámara va a hacer posible que esta iniciativa salga adelante porque creo sinceramente que el partido nacionalista vasco ha decidido retirar en última instancia su enmienda al comprobar que iba

esta propuesta de upyd compartida con algún otro grupo la sustitución definitiva de las pelotas de goma que las pelotas de goma dejen ya

esta es la propuesta progresista de upyd que espero salga adelante quizás

volvemos efectivamente como han dicho otros grupos a debatir aquí un tema que ya se debatió

en el año dos mil doce tras la muerte de iñigo cabacas

y desde este grupo queremos volver a poner de manifiesto nuestro deseo de que se culmine la investigación y que en su caso cuando los hechos estén determinados si hubiera lugar a que se depurasen responsabilidades las mismas se depuren pero cuando se presenta una iniciativa

en primer lugar hay que señalar que seguridad y libertad

que se debe conjugar de forma adecuada una sociedad sin seguridad no es una sociedad libre y por lo tanto debemos de procurar una sociedad

estamos de acuerdo creo que todos que el uso de la fuerza por parte de los diferentes cuerpos policiales debe regirse por los principios de congruencia oportunidad y proporcionalidad

y que también en su caso deben ser utilizados con mesura todos estamos de acuerdo también en que el uso de los medios antidisturbios

el último recurso a utilizar en una actuación progresiva pero todos también o por lo menos todos deberíamos de estar de acuerdo en que a veces el uso de la fuerza por mucho que la ertzaintza o que cualquier otro grupo policial

imprescindible en relación al uso de medios antidisturbios cuando se plantean cuestiones de esta naturaleza entendemos que debe realizarse una valoración del contexto en el que se produce

y debemos hablar por tanto de que es necesario conciliar el uso proporcionado de la fuerza ante comportamientos violentos con el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y lo que no podemos ocultar por mucho que aquí se haya querido vender una arcadia feliz

que no existen grupos que hacen de la violencia su modus vivendi

para utilizarlas como un terreno abonado para que la violencia violencia en ocasiones extrema

tanto de los que participan en la manifestación como de ciudadanos que estaban ejerciendo su vida cotidiana y no estaban formando parte de la manifestación y de los propios agentes

tiene la obligación de ofrecer una respuesta proporcionada a este tipo de hechos violentos y tiene la obligación de restaurar el orden público no podemos permanecer impasibles ante situaciones violentas entre otras cuestiones

del conjunto de los ciudadanos nuestras calles no pueden ser espacios de impunidad por mucho que algunos es lo que pretendan donde los violentos

es verdad que en primer lugar lo que se debe hacer es profundizar en las medidas preventivas como medida disuasoria para evitar así males mayores y actuaciones por nadie deseadas por los primeros que no son deseados son por los propios agentes de la ertzaintza

escenarios que a veces son difíciles de prevenir y que se hace inevitable el uso de la fuerza pero también es cierto y lo hemos dicho en otras ocasiones que ha habido algunos incidentes que se han producido últimamente que eran fáciles de prever y que la organización de los operativos fue

y así podemos poner por ejemplo las imágenes de bilbao durante la celebración de la cumbre económica mundial que fue pasto de los violentos con la inacción de la propia policía siguiendo instrucciones de carácter político o la denuncia que además fue denunciado por los propios sindicatos y por los propios agentes de la ertzaintza allí presentes y se ha denunciado en esta sede parlamentaria o la denuncia de los agentes

donde el número de agentes que se enviaron fueron absolutamente insuficientes

una patrulla para cientos de manifestantes nuestro grupo desde luego no quiere un modelo basado en respuestas desproporcionadas pero tampoco un modelo cuya respuesta sea

acertar a veces con el principio de proporcionalidad no resulte una tarea sencilla porque es verdad y nosotros podemos reconocerlo que una cosa es organizar un operativo en las paredes de una comisaría y otra bien distinta trabajar sobre el terreno pero es que en algunos casos lo que falla lo que es absolutamente mejorable y manifiestamente mejorable es la propia preparación del operativo

al principio mejorar las medidas preventivas mejorar el diseño del operativo a veces resultaría la medida más eficaz

también nosotros lo reconocemos a veces esas medidas preventivas no son suficientes y que por lo tanto hay que actuar ante esos actos violentos la violencia no surge de forma espontánea

tenemos que ser conscientes de que las fuerzas del orden se tienen que enfrentar

a los agentes que se deben enfrentar ante esa violencia

la integridad de todos los ciudadanos y su propia integridad es cierto y nosotros estamos de acuerdo en que estos medios deben de ser lo menos lesivos posibles

lo que quizás debiera comenzar es a interiorizar determinadas pautas de comportamiento porque eso de que ya no existen episodios de violencia en euskadi no sé en qué euskadi vivirá usted señor arzuaga pero los episodios de violencia siguen existiendo y por lo tanto que estos episodios de violencia no existiesen a no tener que utilizar materiales antidisturbios quizás para evitar estos hechos violentos habría que empezar

su existencia y no poner ningún paño caliente a ningún hecho violento si nos empeñamos en buscar subterfugios o justificaciones a la violencia lo que estamos es

algunos países como alemania utilizan los cañones de agua en italia se utilizan los gases lacrimógenos en muchos casos para algunas policías dicen que

según los propios agentes y eso tendrá que evaluarse este material carece de eficacia no es lo suficientemente eficaz para repeler

y no asegura ni la seguridad de los agentes

y no permite actuar con la suficiente como digo seguridad nosotros vamos a mantener

en el dos mil doce la misma otros grupos a lo mejor la cambian nosotros la misma creemos que es necesario que se vaya sustituyendo poco a poco y que se restrinja al máximo la utilización de las pelotas de goma que solo hasta que no se sustituya por otros medios que solo sean las brigadas

lo han dicho aquí que lo que no puede suceder es que la ertzaintza salga

eso no puede ser porque evidentemente no hay que utilizar ante medios ante formas de violencia absolutamente extremas medios defensivos es necesario mantener espacios de seguridad porque a veces

impiden el cuerpo a cuerpo que según muchas policías es infinitamente más peligroso y más lesivo no solo para los propios agentes sino también para los propios manifestantes además también es necesario ver cómo se organiza un operativo porque

no requiere el mismo número de agentes que si se utiliza otro y lo que es cierto es que es verdad que en otros países de europa

existen muchísimos más agentes de los que existen aquí luego

de forma completa y con la organización de forma completa nosotros no íbamos a votar favorablemente a la iniciativa presentada por bildu entre otras cosas porque lo que venía lo que subyace detrás de esta iniciativa

porque vive en ese mundo ideal en el que a todos nos gustaría vivir que no existen medios violentos pero eso

y ante eso ante esa necesidad de mantener el orden público hay que darle

ertzaintza por lo tanto los medios pertinentes pero esos medios

lo menos lesivos posibles y evidentemente nosotros

a favor de la enmienda del partido socialista finalmente ha habido una transacción y también vamos a votar favorablemente que se restrinjan al máximo y que se proceda a la sustitución por otros medios

menos lesivos que evidentemente no causen daños que todos todos lamentamos y que los primero que lo lamentaron fueron las fuerzas y cuerpos

que creo que ha sido quien más ha lamentado evidentemente que sus padres sus amigos y sus familiares los primero

fueron unos de los que más lamentaron la muerte la inexplicable y desde luego
que se tenía que haber evitado la muerte de iñigo cabacas nada más muchas gracias eskerrik asko

en primer lugar como no puede ser de otra manera desde euzko abertzaleak

y expresarle sinceramente que somos conscientes de su dolor y lo compartimos

y en su caso se depuren todas las responsabilidades que se pudieran derivar de aquella situación en este tema tan sensible se trata de encontrar un equilibrio entre la utilización de los medios que puedan tener una mayor efectividad para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público pero con el mínimo impacto lesivo para las personas y todo ello garantizando

utilización ajustada de derecho debemos afrontar este tema con gran sensibilidad solidaridad y comprensión hacia cualquier persona que haya podido ser víctima

se deben exigir todas las responsabilidades posibles y también desde la máxima comprensión y solidaridad hacia los agentes de la ertzaintza que precisan también de medios para garantizar el orden público en todo momento

en supuestos de alteraciones graves del orden público pero a la vez se hace necesaria para asegurar y proteger a los ciudadanos y a los propios agentes si bien estas actuaciones policiales

necesidad y proporcionalidad previstos en la ley de policía creo que nadie puede tener dudas respecto a que el interés tanto de los cargos políticos del departamento de seguridad del gobierno vasco como de los mandos policiales tanto de los actuales como de los anteriores

es evitar o minimizar consecuencias no deseadas para la vida o la integridad de las personas en la utilización del material de dotación policial la ertzaintza

de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía vasca de todos y de todas entendemos que el derecho a la libre expresión y a la libre circulación son derechos fundamentales en una sociedad democrática

de una manera normal y civilizada el problema surge cuando en el ejercicio de estos derecho se vulneran otros poniendo en peligro

incluso de los propios manifestantes entendemos que en esta materia es muy importante el aspecto preventivo a la hora de minimizar riesgos y en esta línea

primero con la adquisición de nuevos materiales menos lesivos y en segundo lugar con nuevas tácticas operativas sí señora gallastegi pasos dados pasos dados por este gobierno a raíz del trágico suceso del cinco de abril le voy a detallar los pasos que iniciaron ustedes y que se han seguido por este gobierno

los responsables políticos y policiales de aquel momento tomaron la determinación

procediendo a la restricción inmediata de las pelotas de goma decisión que también respondía a las propuestas realizadas desde este parlamento contradicciones o no contradicciones nos achacaban el que no tenga ninguna contradicción en su seno que tire la primera piedra

la expresión la metáfora quizás no sea la más adecuada en este tema pueden disculpar

grupo de trabajo técnico de los propios agentes fue dando pasos necesarios para indagar qué tipo de material se estaba utilizando en otras policías europeas analizar sus características

de investigación y comprobación se optó finalmente en el año dos mil doce por el modelo lanzador hk seiscientos sesenta y nueve para ser utilizado con munición

de uso policial adoptado por un gran número de policías europeas

y el proveedor del mismo se fueron recibiendo los nuevos lanzadores entre finales del dos mil doce y comienzos del dos mil trece realizadas las pruebas técnicas pertinentes en la unidad de brigada móvil desde la academia de arkaute se fue organizando e impartiendo la formación necesaria para su uso

y a continuación al resto de las unidades principalmente las de seguridad y protección ciudadana a día de hoy

han recibido formación para el uso de estos nuevos lanzadores con la adquisición de estos nuevos lanzadores las escopetas de bocacha lanzapelotas de goma

regulándose su uso cuya regulación quedó plasmada en la instrucción número setenta y tres del viceconsejero de seguridad que establece que el uso de los lanzapelotas queda absolutamente restringido y es de carácter excepcional

con el objetivo de evitar males mayores hoy día todas las unidades que precisan de su uso disponen ya de los lanzadores hk ciento sesenta y nueve como material de control de masas en situaciones de alteración grave del orden público atendiendo a lo que establece el artículo treinta y cuatro de la ley de policía del país vasco

de seguir realizando pruebas e investigaciones a fin de optimizar su uso homologar municiones menos lesivas y mantener la eficacia de las tareas policiales

son las nuevas tácticas operativas que son aspectos en los que se ha evolucionado en las actuaciones de la brigada móvil a lo largo de estos dos últimos años

y contrastada con la experiencia de otras policías del entorno europeo se han potenciado métodos de interlocución y comunicación hacia los y las participantes en concentraciones de protesta para prever y evitar que estas pudieran derivar hacia conductas violentas más graves y de más riesgo para las personas se ha incorporado en los uniformes el número de identificación del agente de forma visible

para la gestión directa de determinadas formas de alteración del orden público destacando

todo ello acompañado de los cursos de instrucción y formación que buscan optimizar la eficacia policial en el control de las situaciones de desordenes públicos de alto riesgo

así como de la elaboración y actualización permanente de las instrucciones reguladoras

máxima seguridad jurídica en el ejercicio de las funciones que tienen comentadas como garantes de la seguridad pública ante el delito por lo tanto me parece

y más teniendo en cuenta que ha realizado recientemente unas preguntas al departamento que todavía están sin contestar y que hoy me reconocía que no tiene información cómo entonces puede afirmar que no se ha hecho nada aquí tiene datos de que sí se ha hecho algo voy finalizando nuestro deseo creo que compartido por todos

pero desgraciadamente no vivimos en un mundo ideal y pueden producirse manifestaciones violentas

tiene que tener medios e instrumentos necesarios si son menos lesivos y eficaces para garantizar su seguridad y la de todos los ciudadanos y ciudadanas el responsable de mantener el orden público y la legalidad no puede estar indefenso y desprotegido como pretende eh bildu

tal y como manifestó también recientemente la portavoz en el ayuntamiento de bilbao hemos intentado llegar a transacción con el grupo socialista y en vista de que no había posibilidad hemos retirado nuestra enmienda con la intención de apoyar la propuesta del grupo socialista dado que es lo que se adoptó en esta cámara en junio de dos mil doce y en lo que ha estado trabajando este gobierno continuando esa labor

una transacción con upyd y también vamos a apoyarla porque como decía

de lo adoptado por esta cámara en junio del dos mil doce y por el gobierno socialista y en la que se continúa trabajando en la actualidad para que no vuelvan a suceder hechos como este me queda minuto y medio y quería hacer un rápido repaso a alguna de las ocho razones que ha expuesto

me extenderé un poquito más si es posibles decía la primera que son letales y que hay muchos heridos pues

intentar que esto no vuelva a pasar también es cierto que cuando se utilizan estos medios o cuando se utilizaban estos medios antidisturbios también había

están demostrando que se están adoptando medidas para evitar nuevos hechos trágicos como este nosotros sí que entendemos que la ertzaintza nuestra policía integral siempre actúa bajo

pues asumirá las responsabilidades que correspondan evidentemente como decía en tercer lugar ha descendido el nivel de incidentes cuáles son los motivos por qué motivos

y también me reconocerá que la utilización de los medios antidisturbios no ya de las pelotas de goma que como hemos dicho han quedado restringidas de manera

no se están utilizando tampoco de manera abundante como bien decíamos

tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad lo que sí le puedo decir y en respuesta

de una pregunta que hacía sobre los incidentes ocurridos en el dos mil y dos mil doce

de los veintisiete supuestos en trece estimó parcial o totalmente las reclamaciones

en varias ocasiones y creo que usted lo entiende creo que lo entiende lo que pasa que no quiere manifestarlo las instrucciones setenta y tres y setenta y cuatro no se correspondían con lo solicitado por la jueza

a la justicia no se le puede negar no podía ser de otra manera respecto

respecto a la mayoría social y política hoy estamos aquí la sociedad vasca representada y nosotros como decía vamos a apoyar la transaccional firmada por el grupo socialista y upyd

y le animamos me queda un último punto a que se sumen a esta propuesta

jarro de agua fría ciertamente presentábamos esta

traer hoy ya que no creo que es un debate de tecnócratas sino que es un debate que trae un agravio que trae dolor y que trae sufrimiento por detrás y que precisamente

era donde se debía de dar y donde se debía de dar un paso que hoy no se va a realizar el pnv nadaba entre dos aguas prohibir

su palabra dada en el dos mil doce o su palabra en el dos mil quince su palabra en la oposición o su palabra cuando está gobernando y cuando tiene capacidad

y han elegido lo peor y de la peor manera porque retirando su posición

que no tienen posición porque su posición es no tenerla o tal vez cambiarla aleatoriamente en el dos mil doce una cosa en el dos mil quince otra cosa tan aleatoriamente como estas pelotas de goma matan

tal vez upyd que sea upyd quien adopte las decisiones que debía de adoptar el pnv

los mandos intermedios que sean los sindicatos que sean los medios de comunicación que sean los fabricantes de pelotas los que adopten decisiones que no quiere adoptar el pnv es grave el contenido de lo que aquí hoy se decide es grave la forma

asumir sus responsabilidades y no quiere asumir que se decida es grave esa indolencia esa despreocupación por un tema que es tan doloroso y que es tan preocupante la siguiente víctima de las pelotas de goma lo será y lo será

son imprescindibles en la actuación policial antidisturbios y es eso precisamente lo que van a votar por ello

su turno y cada uno defina su posición en su turno

arzuaga jauna por ello con restricción y con sustitución que son las palabras que aquí

lo que realmente consiguen es que no cambie absolutamente nada eso es exactamente lo que

gallastegui cuando dice que no se ha hecho nada eso es precisamente lo que pasa hoy y es que no se da un paso adelante cuando había esa oportunidad no vamos a apoyarlo no podemos apoyar

no supresión señor maneiro no supresión que no aparece en ningún momento de su texto restricción inmediata y sustitución definitiva exactamente lo que tenemos

exactamente es esa la situación que tenemos y por eso nosotros nos vamos a mantener en que es necesario prohibir es necesaria la retirada incondicional que era precisamente lo que las víctimas de las pelotas de goma estaban demandando

el señor maneiro o la palabra que se dejen de utilizar que era precisamente lo que todos los grupos parlamentarios aprobaron en el diputación de bizkaia las juntas generales de bizkaia hacen un llamamiento al departamento de interior del gobierno vasco a que todas las unidades de la ertzaintza dejen de utilizar las escopetas lanzaderas de pelotas de goma ahora va a haber

señora llanos dice nuestras calles no pueden ser espacios de impunidad

lo van a ser las pelotas de goma se volverán a usar

nuevas víctimas que no obtendrán justicia hoy no cambia nada hoy no cambia nada hoy no hemos avanzado en nada

me reconoce que son nuevos tiempos no gracias a ustedes eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria

estoy dispuesta a cambiarle la redacción lo que estamos pidiendo creo que se lo he dicho alto claro y con rotundidad es la desaparición la restricción la prohibición de las pelotas de goma si quiere se lo cambio y cuando se habla de sustitución es muy claro

isiltasuna el diccionario de la real academia de la lengua es muy claro es cambiar una cosa por otra

hablando de costumbres no me hubiera imaginado jamás cuando vine por primera vez a este parlamento

las palabras que tengo que decir porque tengo cierta tendencia a utilizar palabras que no son adecuadas pero lo que nunca hubiera pensado es que

el saber estar y el respecto por el resto de los grupos parlamentarios que

no tiene parangón en primer lugar en ningún momento

que no tenga información es que no la tenemos nadie porque el departamento en vez de darla

pero no solamente en este es en otros también en casi todos y jamás utilizaría yo una conversación privada en el caso de que se diera en sede de tribuna parlamentaria pero

ya ha aparecían cuando el señor unzalu hermosa

el departamento de interior en relación con este asunto es una estrategia global para mejorar sustancialmente

la interlocución con los ciudadanos las medidas de seguridad ciudadana y garantizar los derechos de todos y las libertades de todos

lo que le estamos diciendo a este gobierno para que quede claro es que como ya tenía que haberse dado ya hace tiempo porque casualmente efectivamente

que saben utilizar estos nuevos sistemas que han llegado al departamento pero en el dos mil trece había dos mil y pico

sistemas de control de desordenes públicos y sistema de material antidisturbio no sé qué estamos haciendo

el que hubiera estado gobernando hubieran desaparecido ya para que quede claro señorías lo repito

las medidas que se tomaron eran con un tratamiento paulatino

alguien tiene ciertos problemas para leer porque normalmente es como cuando habla

y así no vamos a ninguna parte lo que les estamos diciendo y lo que estamos pidiendo y creo que es

la seguridad de todos nosotros es que el gobierno retire restrinja inmediatamente sustituya

lanzapelotas actualmente existentes todavía por unos sistemas que no sean letales y que garanticen la seguridad

todos esos cursos de formación que desconocemos cuya información no se nos facilita

continua no vamos a ver hoy si utilizamos cómo lo vamos a hacer y que haya un control mayor de los escopeteros es mejores utilizaciones mejores capacitaciones mejores dotaciones a la propia ertzaina para nuestra seguridad la de todos

desordenes públicos y también para ellos claro como el agua clara pero

la próxima vez no vamos a hablar usted me manda una documentación

un estrado parlamentario podremos tener

y de en fin de educación mínima que se tiene cuando uno está intentando

no por beneficio propio sino en definitiva para que las cosas funcionen mejor y para que se haga lo que se tiene que hacer cuando el gobierno no hace lo que tiene que hacer

yo no he dicho en ningún momento que las pelotas de goma sean básicas necesarias e imprescindibles usted ha debido entender mal he planteado lo que

no esel nuestro no he dicho esto he empezado diciendo que efectivamente las pelotas de goma son el proyectil básico de los cuerpos policiales antidisturbios en españa

para finales de dos mil doce y he dicho efectivamente que el sindicato unificado de policía no ha solicitado su retirada y que este sindicato cree que el uso de pelotas de goma

y solo se usan en situaciones excepcionales pero es lo que piensa este sindicato no lo que piensa upyd y efectivamente he dicho que entre los defensores de las pelotas de goma están quienes aseguran que son imprescindibles para poder disuadir distancia actos violentos esto es lo que yo he explicado pero la propuesta de upyd tanto la enmienda como la enmienda de transacción firmada con el grupo socialista

hoy estamos pidiendo que las pelotas de goma no se utilicen más esto es lo que está escrito en esa enmienda de transacción restricción inmediata y sustitución definitiva es decir que las pelotas de goma no se utilicen más en ningún caso por parte

esto es lo que está escrito hemos querido decir y hemos dicho tanto la portavoz del grupo socialista como un servidor

ha pasado ya demasiado tiempo el portavoz del grupo nacionalistas vascos nos ha hecho un relato

sin embargo insisto queda una actuación que sigue pendiente y que todavía no se ha tomado y que es la que pedimos a través de esta transacción la sustitución definitiva de las pelotas de goma que las pelotas de goma no se utilicen más todo esto que usted relatado está muy bien pero es insuficiente queremos un paso más el paso definitivo que las pelotas de goma no se utilicen del mismo modo que no se utilizan en otros países de nuestro entorno vamos a ver efectivamente puede haber grupos o actuaciones violentas

debe responder tal como algún grupo ha planteado nosotros no estamos planteando ningún tipo de pasividad por parte de la ertzaintza lo que pedimos es que la ertzaintza con el material más eficaz posible y en concreto que se supriman o dejen de utilizarse aquellos instrumentos o materiales excesivamente agresivos y lesivos

que provoca en concreto evidentemente me refiero a las pelotas de goma es decir no estamos diciendo que puesto que no va a haber episodios violentos

estamos diciendo que aunque haya episodios violentos y haya grupos radicales o grupos violentos ni siquiera en esos casos se utilicen las pelotas de goma

feliz y puede haber actuaciones de grupos violentos y ahí la ertzaintza tiene que actuar pero tiene que actuar y es lo que pedimos

de las pelotas de goma tal como se hace en otros países de nuestro entorno de los que tenemos evidentemente mucho que aprender en fin yo me quedo con el acuerdo pienso que va a ser aprobado por amplia mayoría quizás debería aprobarse por la totalidad de la cámara ha habido un grupo que ha decidido

y para hacerlo lo que ha pretendido hacer ha sido manipular burdamente lo que esta transaccional dice en fin cada cual decide qué es lo que finalmente vota
la transaccional y lo que proponemos es meridianamente claro gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias de nuevo señora presidenta lo decía en mi primera intervención este grupo mantiene con respecto a esta iniciativa

exactamente exactamente la misma posición que mantuvo entonces

cierto que hay otros grupos que han variado que han modulado su postura

y otra cosa es estar gobernando nosotros en ese momento apoyábamos al gobierno pero incluso apoyando al gobierno socialista

la posición era la misma porque lo dijimos entonces y lo queremos reiterar ahora creo que en este tema en el que

a veces es fácil hacer demagogia

con responsabilidad nosotros lo dijimos entonces y lo hemos dicho

y lo volvemos a reiterar claro que creemos que se tienen que estudiar otras posibilidades y otras materiales menos lesivos

entonces había una iniciativa y una enmienda socialista similar a la de hoy y nosotros apoyamos aquella enmienda socialista que lo que venía a decir era eso que se restringiese el uso y que se sustituyese por otros medios menos lesivos

y es lo mismo porque lo que usted pretende señor arzuaga es que no haya

hubiese episodio violentos si no hubiera episodios violentos que es lo que creo que deseamos todos que no hubiera ningún medio antidisturbios porque lo que usted pretende y lo ha dicho además aquí en muchas ocasiones es que no haya policía

pero lo es y como le he dicho antes en muchas ocasiones claro que la responsabilidad es suya

muchos actos violentos en los que se ataca como los que pasó en vitoria en los que se ataca con piedras que se ataca con adoquines quitados del suelo

ustedes esos no los condenan no hay episodios violentos ojalá no los hubiera y ningún medio

pero lo es porque existen esos medios violentos que hay que buscar los menos lesivos posibles desde luego

en el que se han lanzado muchísimas pelotas de goma ha habido episodios

son lo absolutamente dramáticos e importantes para que den lugar

pero lo que usted pretendía claramente es que no existan que

responder y eso es inconcebible porque ante episodios violentos la ertzaintza por ley

de restaurar el orden público y la restauración del orden público ojalá se hiciese simplemente con la presencia de los propios agentes ante los manifestantes pero no porque eso volvería ser la arcadia feliz que usted pretende no es que aparece la ertzaintza y empiezan

creo que es necesario dotar de medios lo menos lesivos posibles eso sí para la restauración de ese orden público y se hablaba yo por eso

usted dice que las nuevas no son efectivas no lo sé que se estudien

comparado pero también es cierto que en muchos países se está denunciando que la utilización de cañones de agua es absolutamente lesivo que en muchos países en los que se utilizan los botes de humo

o sino las llevan las lesiones que producen son también muy peligrosas con lo cual claro a la hora de estudiar la sustitución

que sea mucho menos lesivo que el que es ahora por eso nosotros igual que en el año dos mil doce décimos

y desde luego que se acabe y que se impulse su eliminación y su sustitución

en su momento lo apoyamos y hoy volvemos a hacerlo porque creemos que cualquier

aunque solo sea uno es suficiente para que llevemos a cabo este análisis pero también tenemos que decir y queremos terminar confiando

en los profesionales en su buena voluntad porque aquí en muchas ocasiones y ese grupo

vengativa que sale a la calle en lugar de a cumplir con la que la ley le obliga que es a restaurar el orden público y a garantizar a derechos y libertades los suyos y los míos y los de todos los vascos sale

eso no es así con lo cual yo termino haciendo una absoluta

que es como le digo garantizar los derechos y libertades los suyos
y los de todos los vascos nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

bai eskerrik asko presidente andrea señora gallastegi creo que últimamente hemos negociado varias propuestas en este parlamento y creo que mi actitud siempre ha sido con usted clara ir de frente y clara yo creo que hoy

tenia conocimiento de que había presentado preguntas y que todavía no se le habían respondido y me ha respondido usted

ningún tema como para ponerse como se ha puesto peor seria y creo

que ayer intente llegar a una transaccional con usted esta mañana he intentado llegar a una transaccional con usted y cinco minutos antes de tratarse el tema me he enterado que había llegado una transaccional con upyd

la enmienda transaccional yo no se que es más elegante parlamentariamente respecto a lo hecho a lo dicho y lo hecho pues evidentemente lo dicho y lo hecho ahí está y cada uno tiene que asumir su responsabilidad

las explicaciones restricción inmediata y sustitución por otros materiales nuevos menos lesivos buscando la eficacia pero bueno señor arzuaga

en los últimos años y cual sigue siendo su estrategia política sobre la ertzaintza no me voy a remontar a tiempos muy lejanos que han salido la señora llanos y lo ha expresado

calificativos que hoy no voy a reproducir pero ya se han mencionado aquí estamos en un nuevo tiempos sí lo hemos mencionado los dos pero todavía reconozca que no es fácil que tienen que evolucionar mucho

de aquellos tiempos pasados recientemente y en esta línea su portavoz a dicho literalmente que la ertzaintza ha formado de la maquinaria de guerra del estado español

y esto se nota en la actuación de su grupo en el día a día en la propuesta que hacen hoy en la tramitación de los presupuestos generales

eliminar las partidas para vestuario y uniformes también la eliminación me refiero a la ropa ignífuga a los guantes antidisturbios no no se ría matute también la eliminación de la partida para la renovación

protecciones de piernas y brazos como dotación personal de brigada móvil la partida destinada a armamento con la que sufraga el gasto de emunción fundamentalmente para formación en la academia los nuevos tiempos

en el uso de arma reglamentaria como hacen todas las policías europeas incluso

en nuestros pueblos y ciudades y hoy quieren sumar en la misma línea

queda claro que todos los demás grupos parlamentarios le respaldamos y apoyamos y queremos una policía integral que garantice el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía vasca vuelvo a repetir de todos y de todas y finamente se nos presentaba

métodos también se nos presentaba hoy aquí como un defensor de los derechos humanos

hasta ahora dónde estaba dónde estaba cuando los agentes de la ertzaintza se les quemaba vivos

en aquellos casos no era por error no era por error o sí era por error

les asignaba a ellos a los ertzainas y a los que pensaban de forma diferente periodistas jueces políticos etcétera dónde estaba defendiendo los derechos humanos

dónde estaban ustedes está hablando con un representante del partido nacionalista vasco

viejo porque va a cumplir ciento veinte años viejo pero con principios y sano y fuerte como un roble

yo con el grupo eh bildu no he mantenido ningún tipo de contacto yo lo que tenía que hablar lo he hablado con algún representante del grupo socialista y

en sus términos porque quien quiere entenderla la entiende perfectamente

he hablado con algún miembro del grupo socialista bai gallastegui andrea

por lo tanto cuando me refiero a la modificación del texto le estoy diciendo de nuevo

que en la labor de control del cumplimiento por parte de mesedez gallastegui andrea porque es donde nos veremos en cualquier caso

bai edo ez no porque además reglamentariamente no se puede cambiar